permítanme iniciar mi sesión de la tarde con

en una comisión del senado norteamericano en la que el senador pastore

preguntándole por la utilidad y aplicación práctica de la física de partículas hoy nadie se preguntaría por ello

y le decía el senador pastore pero hay algo relacionado con este acelerador que de alguna manera ayude a la seguridad del país a lo que el doctor wilson contestaba no señor no lo creo

y el doctor wilson volvía a contestar nada en absoluto y el senador pastore

dijo solo tiene que ver con el valor que nos otorgamos los unos a los otros

nuestro amor por la cultura nuestro amor por el conocimiento tiene que ver con todas esas cosas tiene que ver con buenos pintores buenos escultores

quiero decir todas esas cosas que las personas respetamos veneramos y queremos en nuestro país y por lo que somos patriotas

excepto en hacer que merezca la pena defenderlo esa es justamente señorías la esencia de nuestro pacto hoy

en nuestra comunidad científica vasca proposatzen ari garena gaur

ikerketarik gabe ez dago etorkizunik la investigación de élite es la escuela de los innovadores de mañana

no puede haber un desarrollo tecnológico ni una economía fuerte sin una infraestructura de investigación científica y tecnológica que le sirva de base hoy en día es comúnmente aceptado que la posesión de unos buenos equipos de científicos en las diversas ramas de la ciencia

como aplicada permite no solo un gran avance en la propia capacidad de creación e innovación sino una mayor rapidez en el aprendizaje y adaptación de innovaciones tecnológicas externas por lo tanto señorías la ciencia es la base de la innovación es la base de nuestro sistema productivo por tanto señorías he de decirles que este

es de la época de carlos garaikoetxea la industria este también lo es

el gobierno invierte debería hacerlo en el futuro la economía europea señorías puede encontrarse en coyunturas

los países más prósperos son aquellos que siguen invirtiendo en investigación al margen de la coyuntura económica en la que se encuentran así lo están haciendo alemania noruega

que año tras año de una manera consistente

entre un tres y un seis por ciento y es que señorías la prosperidad se ha concentrado en aquellos lugares en los que el conocimiento ha permitido aprovechar los recursos existentes y la historia como bien saben ustedes nos muestra abundantes ejemplos no solo en la historia antigua

a los países bajos que aprovecharon el oro y la plata de las américas que no

y tienen ejemplos contemporáneos lo cierto es que no es casualidad que

surja precisamente en alemania y en gran bretaña en el reino unido porque fue allí precisamente donde se generalizó donde se generalizó

primaria casi nada doscientos años antes de que nosotros pudiéramos hacerlo y fue precisamente allí donde desde el siglo diecisiete se produce un desarrollo científico en las universidades que se han apartado ya del paradigma medieval

con newton y fue en alemania donde la universidad humboldt declara su autonomía como institución así que en europa mientras

aquí incluso se cerraron alguna universidad menor como

prósperos como el real seminario patriótico de vergara donde

pero ciertamente no pudimos asistir a la creación de una institución universitaria hasta finales del siglo diecinueve con la universidad de deusto la escuela superior de ingenieros de bilbao y más tarde hasta mil novecientos sesenta y ocho donde asistimos a la universidad de bilbao y en mil novecientos ochenta y uno

todos los gobiernos de euskadi hemos venido haciendo esfuerzos

ese déficit de haber llegado tarde relativamente tarde a la ciencia y además ser un país pequeño todos los gobiernos de euskadi no obstante todavía tenemos un déficit en lo que significa el desarrollo científico hoy todavía en buena medida y más allá

ciencia y tecnología en diversos lugares del mundo básicamente seguimos viviendo de conocimiento exógeno básicamente lo seguimos haciendo y es porque nuestro sistema adolece de un menor tamaño en la parte que se corresponde con la investigación básica euskadi señorías

nunca va a poder competir en términos cuantitativos tiene que buscar por tanto la primera línea por su valor añadido

por lo tanto para mantenernos y teniendo en cuenta

rápido que los demás porque los demás también se mueven necesitamos crear conocimiento necesitamos mayor cantidad de formación

y la sostenibilidad de las cuentas públicas teniendo en cuenta nuestro panorama de envejecimiento de la población necesitamos conseguir que el conjunto de la población trabaje con mayor competitividad mayor productividad uno de nuestros principales desafíos es el de garantizar la continuidad en la llegada de los recursos a la creación del conocimiento ese es una de las primera condiciones que tenemos que atender

e investigación constituyen un binomio inseparable

mayor desarrollo económico y sociedades con mayor desarrollo económico más cantidad de conocimiento por tanto señorías nos falta mucha investigación por hacer y si bien hoy igual que lo fue hace unos años el término de moda

igual que hace unos años como digo fue calidad total hay que distinguir entre lo que significa la innovación de manera genérica de lo que significa una innovación radical producto

esta es una cuestión capital porque solo competiremos por valor añadido y señorías innovación pues es prácticamente todo el desarrollo de productos lácteos es innovación

una innovación radical significativa la que nos permite competir en valor añadido esa se desarrolla con una fuerte base de conocimiento

importar de otros lugares necesitamos haber desarrollado ya

por lo tanto necesitamos huir de la aplicación de lo inmediatamente útil y que conoce en este presente

la idea de que la clave de todo es la innovación de que todo gira de manera genérica en torno a la innovación porque con esa receta señorías entraríamos

tremendamente caduca porque lo que necesitamos de verdad es optar por esas innovaciones radicales por ese conocimiento que hemos de crear

y en el resto de agentes del sistema vasco de ciencia y tecnología

señorías la investigación es precisamente aquella que transporta traslada traduce los recursos económicos en conocimiento

hace justamente lo siguiente es decir traducir el conocimiento de nuevo en productos interesantes para el sistema productivo económico

armónico entre ciencia básica ciencia aplicada desarrollo tecnológico e innovación pero bien previsto que nosotros tenemos un déficit claro en la ciencia básica es decir que así como somos un país

hay que seguir siéndolo tenemos que aportar tenemos que proveer a nuestro país de lo que significa la fuente de conocimiento y para ello tenemos que engrasar bien a todos nuestros agentes que hacen conocimiento como ustedes saben la investigación no es un lujo de países ricos con excedentes sino que es un requisito para ese desarrollo y además la universidad del país vasco y esta es una cuestión relativamente poco conocida

obtiene retornos inmediatos en forma de fondos competitivos para el país vasco

así que una selección una investigación bien

bien evaluada un desarrollo bien evaluado es rentable por tanto hemos de proceder a procesos de selección financiación muy exigentes pero esos procesos darán como resultado a corto plazo también

darán retornos inmediatos que nos importan al sistema así que casi concluyendo

solo seremos un país competitivo a escala global si parte del conocimiento en que se basa la competitividad

entre un descubrimiento científico y su traslación al mundo económico es cada vez más breve como ustedes pueden comprobar en todo el conocimiento que está disponible

los países y regiones del mundo con sistemas de innovación más avanzados nos confronta con un modelo que se repite de manera casi mimética y que toma

la parte emergente que se transforma en aplicaciones novedosas se apoya en un sistema menos visible para el mercado pero muy superior en tamaño

trabajando en laboratorios muy bien equipados y financiados integrados en las mejores redes del conocimiento del mundo cualquier país

sin apoyar su sistema de innovación en un sólido sistema de ciencia y tecnología está abocado al fracaso

a concluir con lo que me parecen las cuatro condiciones fundamentales para ese desarrollo científico la primera es

de la llegada de los recursos a la creación de conocimiento esta es una cuestión fundamental porque un equipo de investigación bien consolidado cuesta hasta diez años lograr y puede morir por inanición

así que continuidad en la llegada de los recursos a la creación de conocimiento un equilibrio y esta es la segunda condición sin macrocefalias un equilibrio entre la investigación básica

el desarrollo tecnológico y la innovación en este momento nuestro sistema adolece de una macrocefalia en el último lugar de la cadena tercera cuestión en nuestro caso como digo consecuentemente un mayor esfuerzo en la investigación básica nosotros no nos podemos permitir el lujo de que si en dos mil doce

estábamos en un dos coma doce hayamos bajado en el dos mil catorce al uno coma noventa y tres en nuestra inversión

hemos de superar eso entre todos y queremos superarlo además

y la cuarta es obviamente y también como consecuencia consistencia permanencia coherencia en nuestra política científica y por eso este pacto señorías por eso este pacto este pacto pretende recoger la voluntad de todos los grupos parlamentarios representados en esta cámara y que representan al país

he de decir que todos nosotros hemos buscado genuinamente este pacto

hemos querido que el grupo nacionalista entre hasta el final todavía tenemos tiempo así que

y vayamos a ello porque la cuantía no era precisamente el tema más

adostutako proposamena en los tiempos más oscuros de la crisis argentina del corralito hubo una pintada

que decía políticos basta de realidades queremos promesas y es verdad que no seré yo quien defienda el hacer promesas que luego no se puedan cumplir

a veces o casi siempre le corresponde también una responsabilidad de liderazgo una responsabilidad de marcar objetivos estratégicos de aglutinar fuerzas en torno a esos objetivos estratégicos y también de garantizar y de aportar los recursos necesarios

del país evidentemente en el ámbito presupuestario es su competencia a las instituciones públicas les corresponde el liderazgo en una serie de ámbitos efectivamente en colaboración con la sociedad

claro y en algunos aspectos tiene que ejercerse con eficiencia y uno de ellos es el ámbito que nos atañe tenemos un plan de ciencia y tecnología que afronta

tal y como nos gustaría al cien por ciento pero que puede ser un instrumento válido

pero que a nuestro entender ha nacido cojo en cuanto a su dotación presupuestario ez da lehenengo aldia hau hemen aipatzen dena baina

de financiación incluidos en el plan de ciencia y tecnología dos mil veinte no estaríamos en ese tres por ciento no voy a entrar al bombardeo de cifras aunque esta cuestión es

la inversión en investigación y desarrollo ha descendido en esta comunidad que estamos en un uno coma noventa y nueve por ciento del pib es

con la diferencia de que china multiplicado por tres en los últimos veinte años el porcentaje que dedica a esta cuestión estamos lejos del tres por ciento que marca la unión europea como referencia estamos lejos del tres por ciento de países como finlandia dinamarca suecia

entzuten diren mezu triunfalistak euskal herria o la comunidad autónoma vasca no es un líder mundial en investigación y desarrollo

pero tampoco es en lo que hace referencia al esfuerzo que dedica a esta cuestión importantísima

calificó al ver los datos reflejados en el plan de ciencia y tecnología

el conseguir el objetivo del tres por ciento al hilo de los compromisos que se reflejaban en ese plan seamos realistas ni vamos a tener un veinticinco por ciento de peso de la industria en el pib ni vamos a tener un tres por ciento

en esta vida a veces hay cosas que se escapan de nuestro alcance hay cosas que no podemos conseguir podemos intentar hacer algo

las cosas no salgan como queríamos pero desde luego lo que sí es nuestra responsabilidad es hacer dar lo mejor de nosotros y de nosotras para conseguir los objetivos que nos marcamos y en este sentido si realmente queremos subir el listón

es necesario que eso se vea correspondido con una apuesta real y que tenga su correspondiente reflejo términos presupuestarios seguramente se nos hablará también de la responsabilidad del gobierno central en el descenso de la inversión en

como ha sido el tren de alta velocidad el gobierno central invierte exclusivamente en el territorio de la comunidad autónoma vasca

del gobierno central en esta comunidad y eso supone que sí hay un coste de invertir

lo que se invierte aquí no se invierte en otras cosas por lo tanto para este país

sean en el ámbito del tren de alta velocidad y no sean por ejemplo

la financiación del tren de alta velocidad como decía antes se trata de coste de oportunidad cañones o mantequilla como decía

hay que elegir y hay que dar prioridad y la política es desarrollar las elecciones adecuadas si queremos

que consiste en pensar que porque hay un tren porque hay una carretera porque hay un puerto

lo cual es un profundo error o si pensamos que la única forma de que haya una buena cosecha es sembrar y que sembrar empieza por invertir en tecnología en ciencia

millónes perdón seiscientos trece cuando el objetivo del tres por ciento exigiría invertir setecientos noventa y tres hay un treinta por ciento menos

y la propuesta de hoy lo que trata es de paliar este déficit hemos recibido o recibimos unas propuestas del psoe que nos parecían buenas en sus términos generales que situaba muy bien el debate

de propuestas por nuestra parte que creo que la convierten en algo mejor todavía

hazi arazi en la historia reciente de euskadi la orientación al desarrollo

la razón es que había y sigue habiendo una conciencia generalizada de que no puede lograrse el progreso

sin la apuesta por la investigación desarrollo investigación a este campo ha dedicado activamente significativos recursos la administración vasca

la sociedad en general y el conjunto de fuerzas políticas compartimos esta apuesta constante del gobierno vasco no hace falta por lo tanto ningún pacto al respecto puesto que este consenso ya existe y todos los reconocemos

la inversión que hoy sigue haciendo el gobierno vasco en investigación es muy superior al de otras comunidades autónomas

en su red de ciencia el programa de captación de talento los grupos consolidados las becas de formación de investigadores el plan universitario que permite tener la universidad pública

en términos de ratio profesor alumno etcétera el pasado dieciséis de diciembre el gobierno vasco aprobó el plan de ciencia y tecnología innovación dos mil veinte estamos

demasiado pronto incluso para evaluar hoy en este parlamento un plan

tenemos al partido socialista que nos ha traído la proposición no de ley que estamos abordando

cuenta con los siguientes objetivos y con la siguiente financiación aunque creo que todos ustedes ya lo conocen su objetivo es el de mejorar el bienestar

y el empleo de la sociedad vasca mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y la mejora de la eficiencia del sistema de ciencia tecnología e innovación en plan de ciencia tecnología e innovación prevé una inversión pública privada de once mil cien millónes de euros entre dos mil catorce y dos mil veinte

millónes de euros significan una apuesta decidida y necesaria por la investigación y la innovación una inversión

y medio plazo porque fuera parte de la coyuntura es nuestro modelo de gestión es el modelo de gestión de euskadi como empresas como universidades y como país

un tercio de esta inversión correrá a cargo de las administraciones públicas de los cuales el gobierno vasco aportará dos mil setecientos treinta y siete millónes de euros

millónes aproximadamente el sesenta por ciento serán aportados por las empresas para la financiación de los proyectos de investigación e innovación empresariales y el resto es decir ochocientos catorce millónes de euros serán financiados

por parte de empresas multinacionales en definitiva el plan

la inversión público privada entre el año dos mil catorce y el año

el crecimiento previsto en dicho plan es financiación pública tasas de incremento medio anuales del dos por ciento para los años dos mil quince y dos mil dieciséis y se estima un crecimiento del cuatro por ciento medio anual durante los siguientes años dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte

para generar confianza en inversores o en ciudadanos y ciudadanas apostamos por mejorar euskadi apuesta por mejorar

por ser más fuertes por crecer en relación a la investigación fundamental el plan de ciencia tecnología e investigación plantea aumentar el peso de la inversión

hasta alcanzar el quince por ciento en el año dos mil veinte con el fin de contribuir a este ambicioso objetivo el plan universitario dos mil quince dos mil veinte movilizará

euros hasta el año dos mil dieciocho superando esta inversión a la prevista en el plan universitario anterior en cuatro millónes de euros estos datos creemos que deberían de estar a la cabecera deberían de estar por encima de todos los textos que hoy tenemos sobre la mesa por un lado la pnl por otro lado la

eh bildu es complicado por lo tanto atender la posibilidad de hablar de modificaciones

acuerdos como a los que se refiere la señora celaá sobre un plan que acaba de nacer sobre el plan de ciencia tecnología e investigación incluso sobre el plan

el grupo socialista nos plantea un pacto un acuerdo para incrementar en al menos un cinco por ciento la financiación en investigación el pacto el acuerdo ya existe no hace falta que ninguno de nosotros ninguno de los grupos aquí presente nos atribuyamos dicha iniciativa

a través de los instrumentos adecuados que lidera el propio gobierno como son los propios presupuestos generales de la comunidad autónoma el plan de ciencia y tecnología el plan universitario

económicas adicionales al plan las previsiones de crecimiento de nuestra economía marcarán los recursos que dispongamos para poder hacer crecer esa inversión que de poder hacerse se hará pero siempre en base al cuadro de financiación que va desde este ejercicio hasta el próximo año dos mil veinte si hay recursos podremos abordar

la marcha de la economía en un tema tan importante como este con una asignación presupuestaria tan sólida no podemos entender que quieran incluir una financiación

en las previsiones que ya se hicieron hace cuatro meses cuando se aprobó dicho plan el gobierno trabaja desde el máximo rigor presupuestario y no entendemos esta necesidad de entrar

de cerrar y además con acuerdo de los agentes implicados en materia de investigación agentes que son los que desarrollan la propia investigación

y felicitar a los agentes implicados y al propio gobierno vasco porque su búsqueda esa búsqueda de acuerdo tanto en el plano universitario en el consejo vasco de la ciencia

en definitiva por haber marcado el camino que permitirá a este país que permitirá a euskadi seguir compartiendo nuestra visión de qué es lo que nos hace y hará más fuertes

a empresas y a personas es decir en general a euskadi eskerrik asko

mis primeras palabras hoy en esta intervención sean de felicitación y reconocimiento al profesor martín massó que ayer mismo fue galardonado

profesor titular de neurología médica en la universidad del país vasco y jefe de servicio de neurología

de san sebastián cuya labor investigadora es fundamentalmente aplicada y orientada a resultados bien como estamos hablando de investigación antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley que se somete a votación

porque a modo de pequeño estado de la cuestión junto con los datos

si bien es universalmente reconocido que el esfuerzo en investigación y desarrollo se traduce a medio plazo en un aumento del producto interior bruto de un país yo no sería tan categórica afirmando que los países más ricos y desarrollados

sino que lo son por haber apostado más que el resto

y tampoco diría o afirmaría sin matices que la ciencia

para el futuro y la empresa para el presente únicamente sin duda riqueza e investigación son dos variables correlacionadas

esa relación se da en sentido inverso y que cuanta más

hay también es más fácil invertir en investigación usted señora celaá afirma que los países no invierten más

invertido sí pero no del todo también se invierte más en la medida insisto en que hay más recursos presupuestarios y se hayan generado o no gracias a la investigación

sino de empobrecimiento lo que es sí o sí es un recorte y lo que ha hecho el gobierno vasco en esta legislatura

recortar en investigación en dos mil once era del dos coma doce del producto interior bruto y dos años después del uno coma noventa y nueve por ciento según el eustat

con incrementos anuales del tres al seis por ciento de un presupuesto al anterior y lo hacen al margen de la coyuntura económica esa coyuntura económica a juicio del partido popular no es ni parecida dependiendo a qué país nos refiramos y nosotros consideramos que condicionan y mucho los presupuestos también los de investigación ahora bien

a los parámetros europeos que marca

y entiendo que el gobierno vasco también trabaja y se mueve en estas

en su plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación dos mil trece dos mil dieciséis

que sí se va a volver a presentar de candidato pero también habló de ciencia

que piensa mantener o es su voluntad siempre y cuando las condiciones

lo permiten desde luego creciendo como está previsto a un dos coma nueve por ciento desde luego lo van a permitir y si en euskadi también se crece a un ritmo similar también debería ser posible

económica como dice su justificación y su propuesta original ahora bien en la transacción que presentan sí vemos dos matices antes ausentes ya no es un cinco por ciento anual de incremento mínimo ahora se habla de un

de media anual en un ciclo de cinco años y todos sabemos hacer medias y todos sabemos lo que es una desviación típica y eso da un margen también de maniobra

sí hace compatible su propuesta con la situación presupuestaria actual y la previsible para los próximos años si la coyuntura lo permite por eso podemos sumarnos y apoyar

con esa redacción un incremento de recursos económicos destinados a la investigación sí que es inevitable que estén asociados a la coyuntura económica porque si no cómo justifica su grupo no haber hecho prevalecer esta demanda en su negociación presupuestaria

hoy los vascos percibimos más beneficios derivados de la ciencia y tecnología que hace dos años sin embargo el interés científico ha sufrido un leve descenso

la energía y la alimentación y son los científicos y los médicos los profesionales más valorados es lo que arrojan los datos de la última encuesta de percepción social

este mismo estudio concluye que a los vascos nos interesa más la ciencia

los sucesos y gracias a dios los temas de los famosos sin embargo más que por la ciencia los vascos nos interesamos por el empleo

o la política hay un claro oscuro también en este estudio que relaciona la ciencia y la investigación con la edad y el género

es bueno para el presente y también para el futuro de la investigación lo oscuro que hay una brecha de género muy significativa

interesados por la ciencia y la tecnología esta última cuestión debiera corregirse sin duda con políticas públicas decía severo ochoa que la investigación

más cabezas que medios pero medios y recursos es evidente que cuantos más mejor al margen del apoyo que mi grupo parlamentario va a brindar a su enmienda transaccional sí no se ha llamado la atención que estando tan frescos tan recientes

debates y acuerdos en esta cámara como es el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho con un debate monográfico el veinticinco de febrero con sus propuestas de resolución

entre nacionalistas y socialistas sea ahora cuando se aborde la iniciativa del partido socialista esta cuestión pero en cualquier caso la vamos a apoyar porque estamos de acuerdo en hacer un esfuerzo inversor económico si lo permiten las previsiones
que hay para el futuro gracias eskerrik asko ruiz andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria

su apoyo a la propuesta y tranquilizarle en un sentido en que la voz del grupo socialista siempre ha estado en la defensa de estas ideas tanto cuando ha defendido los presupuestos como cuando ha defendido

y lamentablemente no ha podido defender el pcti porque no se correspondía con ser miembro de su consejo lo cual me permite vincular mi intervención con la intervención de la señora corrales porque la señora corrales lo que me viene a decir es que

es decir todo para el pueblo pero sin el pueblo o sea un absoluto paternalismo ya lo hemos decidido en otro lugar ya lo hemos decidido

que hoy estamos hablando fundamentalmente de ciencia estamos hablando fundamentalmente de

estamos hablando de esto la aplicación de ese conocimiento para que pueda ser aplicado es necesario que se cree

más fundamentados en lo que significa la innovación el desarrollo económico etcétera estamos hablando de la primera parte de la parte anclada de la parte grande

pero sin el cual no habría parte emergente no habría parte

me sorprende señora corrales que ustedes no hayan sido capaces de verdad lo digo se lo digo genuinamente y con toda buena voluntad de haber dicho mire usted puesto que lo que va parecido o abunda

vamos a sumarnos todos a ese pacto porque que se pretenda por parte del grupo nacionalista convalidar lo que ha sido discurrido

por lo que significa un acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en este parlamento es lo que me parece escasamente político y eficiente para el país sí usted me dice

que el cinco o el cuatro por ciento no ha sido objeto de cuestión

de alguna manera sacar el balón del campo poniendo la base del dos mil dieciséis y señora ruiz no tema porque efectivamente nosotros aprobamos juntamente con este gobierno es decir les acompañamos

el cual también tuvimos obviamente nuestras reivindicaciones en relación a la investigación pero es el dos mil quince el que se toma como base el dos mil quince

eventualmente a poder construir un presupuesto para el dos mil dieciséis es el que cae dentro de nuestra responsabilidad habrá otro gobierno habrá otro parlamento y obviamente nosotros somos responsables de los elementos que tenemos en presencia por eso

pero obviamente no vamos a renunciar a la posibilidad que tenemos como grupos parlamentarios de formular un pacto de país un pacto de país por la ciencia

señora por la ciencia para que efectivamente pueda ser la base

económico y por qué no oiga qué les molesta a ustedes si ustedes pueden ser parte del pacto si ustedes están llamados a ser parte de ese pacto y usted me dice oiga no hace falta que usted se atribuya palabras textuales dicha iniciativa pero oiga

un agente activo político de este país igual que el resto

y soy miembro de este parlamento igual que estos señores que estos que estos igual y usted ha formulado un acuerdo

absolutamente legítimo eso no quiere decir que no podamos traer nosotros a este foro en el que estamos todos representados un acuerdo de país que lo impulse y usted sabe que la cifra no era el problema usted

voy a concluir tendría muchas más cosas para decirles no quiero decir cosas que en fin en fin pero simplemente

voy a concluir con algo que oiga las universidades si todo está tan bien

de qué se quejan oiga los científicos si todo está tan bien pero de qué se quejan esos señores solamente voy a concluir con una frase además del papel clave como inversor director en ciencia y tecnología

para ello tiene mecanismos que van desde apoyar líneas estratégicas de investigación fundamental

es importante que los políticos se persuadan de la importancia que tiene para el futuro de euskadi

que tenga como objetivo la generación de crecimiento y empleo a través de la ciencia señorías aquí no se trata

estamos invirtiendo lo bastante la pregunta fundamental estamos invirtiendo bastante como para cambiar y modificar nuestro desarrollo económico y aportar empleo a la población vasca empleo en empresas intensivas en conocimiento esa es la pregunta señoría y yo creo que es corresponsable hoy apoyar esto y si usted quiere fíjense el cinco por ciento de la media usted puede ahí maniobrar

nere ustez ez da nahikoa yo creo que se necesita bastante más

que tiene como objetivo fundamental garantizar un mínimo un suelo pero creemos que si realmente somos conscientes de la situación que tenemos la situación socio económica que tenemos de las necesidades que tenemos aquí lo que debería haber es una reflexión quizás todavía más profunda de la de hoy

ese plan puede ser un punto de partida pero ese plan tiene que ser mejorado

no solo porque este parlamento no haya dado su opinión sobre este plan y hayan quedado algunos grupos y algunas opiniones fuera sino porque además

de la inversión pública y evidentemente también desde la privada

también hay unas proyecciones sobre lo que se puede invertir desde el sector privado sobre la que no hay tanta garantía

tal y como se plantean pues evidentemente me genera muchas dudas muchas dudas ya digo no por la estructuración de la red de ciencia y tecnología sino porque realmente los recursos

yo creo que aun así incluso aunque hoy aprobemos esta petición de incremento de garantía de incremento anual del cinco por ciento

porque tenemos un modelo productivo que no está a la altura

nos podemos quedar fuera de juego la autocomplacencia es suicida

no significa ir proclamando a todas horas que es el mejor país del mundo en todo

que digamos euskadi es el mejor euskal herria es el mejor los que más investigamos

seamos conscientes de la realidad y la realidad no es esa la realidad es un país que tiene un problema que invierte un dos por ciento que es muchísimo menos de lo que invierten los países más competitivos del mundo y teniendo en cuenta además que somos un país pequeño y especializado y por tanto el desfase entre nuestra inversión actual y la que debíamos tener es un desfase grave

este crecimiento del cinco por ciento anual por lo tanto aquí tenemos un problema eta gaur bidali nahi duguna gizartera lehen esaten nuen moduan mezu argi bat da

que se garantice un incremento del presupuesto de la universidad anualmente no hemos entrado en concreción porque evidentemente corresponde a otros ámbitos de debate el cuantificar y

cómo se va a traducir en la práctica ese incremento pero lo que no se puede estar diciendo es que apostamos por una sociedad del conocimiento

como la nuestra que es la universidad pública quede a expensas de los vaivenes presupuestarios y no tenga garantizado que cada año como elemento estratégico que es de la construcción

no tenga garantizado un incremento presupuestario y esto es lo que en esta propuesta se pide y se va a aprobar hoy aquí también queríamos hacer mención

queríamos hacer también una apuesta por las grandes pequeñas y medianas infraestructuras investigación en este país cuando se habla de infraestructuras se piensa automáticamente en cemento pero si queremos jugar la liga de la tecnología en primera división tenemos que hacer apuestas también por infraestructuras importantes de investigación a todos los niveles y finalmente no quería terminar sin mencionar una cuestión que hemos logrado introducir en esta propuesta que es la garantía

al papel y a la situación laboral en las que están muchos investigadores porque la triste realidad de este país es que a pesar de que sea un sector prestigioso muy bien valorado en la sociedad hay muchos investigadores

que a día de hoy viven en la precariedad encadenando becas y con una situación de absoluta inestabilidad y por tanto hay que tener en cuenta que también existe precariedad laboral y necesidad de mejoras en este sentido en general como decía antes teníamos una propuesta buena creo que ha mejorado a raíz de las enmiendas y creo que es una buena señal a esta sociedad
de por dónde tiene que ir aunque hay que seguir trabajando y profundizando en esta línea eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

efectivamente señora celáa el gobierno vasco puede ser

del pacto y así lo ha sido en sus treinta años de vida del color que haya sido el gobierno vasco ha estado en los acuerdos que en materia de investigación se han tomado porque qué es un pacto un pacto se toma cuando hay problemas un pacto

se toma entre todas las partes cosa que usted señora celáa en el día de hoy no va a conseguir porque no vamos a apoyar ese primer punto un pacto es necesario cuando las cosas no funcionan trabajando entre todas las partes por lo tanto este gobierno ha sido parte de todos los acuerdos que en materia de investigación se han tomado en los últimos treinta años aunque creo que también usted mezcla bastante pacto de país pacto

podrán tomar acuerdos pero un pacto de país no podrá ser tomado en este parlamento porque creo que todas las instituciones no están representadas

por lo que y avanzo cuál va a ser el sentido del voto de nuestro punto número siete que avanzo también pediremos el voto la votación por puntos en el número siete

pero hace referencia a seguir trabajando en política de investigación y va acorde

en ese punto no es el modo

usted pide un pacto un acuerdo para aumentar en al menos un cinco por ciento la financiación en investigación y le vuelvo a repetir porque creo que es totalmente necesario dos cosas el acuerdo ya existe desde hace

de los instrumentos adecuados que lidera el propio gobierno

y el plan universitario plan de ciencia tecnología e innovación lo aprueba un órgano plural de amplio espectro

compuesto por los diputados generales los consejeros de salud desarrollo económico y competitividad y educación rectores de las universidades vascas

un acuerdo en el momento hubo un acuerdo en el momento en el que se aprobó dicho plan y el plan universitario fue objeto de debate en este mismo parlamento y se enriqueció con las propuestas de resolución aprobadas en esta misma sede a la que ustedes también a través de la enmienda transaccional quieren enmendar en a través de su punto número dos como ha dicho el representante de bildu ampliando duplicando

lo que se aprobó también no hace ni tres meses en el consejo de gobierno y que pasó

someterse a propuestas de resolución estas son señora celaá las herramientas adecuadas para establecer las pautas de inversión que requiere

presupuestaria un aumento de al menos el cinco por ciento como dice usted en investigación a través proposición no de ley como es en el día de hoy porque lo que está haciendo usted es también hurtar el debate presupuestario y quebrar el consenso que ya se obtuvo en las citadas herramientas en el

y a la hora de aprobar el plan universitario

señor representante de eh bildu de que no tiene ningún sentido son planes aprobados consensuados entre todos los agentes e instituciones y

que tiene la misión dichos planes tienen la misión de optimizar los recursos existentes hay por lo tanto acuerdo sobre el incremento de las aportaciones en los mismos planes escrito dichos incrementos anuales que se van a dar en cada uno de ellos

es preciso como proponemos por lo tanto en nuestra enmienda de totalidad seguir invirtiendo

hasta ahora tal y como ha venido haciendo el gobierno vasco hasta ahora con el fin de dotar de estabilidad a estas políticas que han sido y seguirán siendo bajo la dirección de este y de sucesivos

exclusivamente por cortesía parlamentaria porque
toda proposición no de ley toda la transacción configura un todo nada más y muchas gracias celaá

sí muchas gracias señora presidenta y buenas tardes a todos traemos una propuesta para la introducción

en lanbide pero me van a permitir dado que acabo de conocer leyendo un medio de comunicación una noticia que es de máxima relevación de actualidad porque viene ni que al pelo

pero seguramente estará publicado en todos los medios de comunicación y también lo estará en todos los medios

si no esta noche mañana mismo esta noticia dice lo siguiente agentes de la policía nacional han detenido en bilbao

en ayudas del servicio vasco de empleo con una identidad suplantada además ya había percibido

como beneficiario de la renta de garantía de ingresos y ayuda a la vivienda con su identidad real también dice los agentes

constataron que dicha persona había cobrado ayudas desde el año dos mil diez

de este dinero cincuenta mil ochocientos cincuenta y dos los había recibido con su verdadera identidad

en su permiso de residencia temporal por ser beneficiario de la renta de garantía de ingresos a la vivienda sin embargo los cuarenta mil setecientos seis euros restantes los había cobrado mediante una identidad suplantada

que le fue intervenido por los agentes y que se encontraba falsificado antes de continuar

diría a continuación exactamente lo mismo de este ciudadano quien se trata en este caso de un ciudadano nigeriano

de cualquier ciudadano con ocho apellidos vascos lo mismo exactamente lo mismo diría lo mismo de una persona que lleva

de una persona con tres generaciones de la calle dato de vitoria lo mismo

porque lo importante es hablar de un sistema en lanbide que permite mejorar un problema que sucede todos los días y parece efectivamente que las ocasiones las pintan calvas en esta ocasión tenemos

esta noticia que refleja un problema un problema que es real que no se puede esconder en un cajón que no se puede meter debajo de la alfombra un problema simplemente que está constatado en que hoy en euskadi

se puede incumplir el principio de una persona

insisto en esto porque para mí es sustancial me importa un pimiento si el ciudadano al que han detenido defraudando a lanbide es un ciudadano nigeriano como si fuera de veinte generaciones del país vasco me importa un pepino el problema es que sucede

no se mantiene el principio de una persona una identidad los ciudadanos cuando mañana ya en cualquier rincón de euskadi cuando mañana lean esta noticia en las ediciones en papel o hoy mismo

se van a hacer una pregunta supongo que es la pregunta que me hago

las nuevas tecnologías permiten en todo el mundo que efectivamente el principio de una persona una identidad quede garantizado

en las oficinas de aguirrelanda todos los agentes tienen que poner el dedo

en un dispositivo de huella digital si

van a tener como sistema de acceso de todos los empleados públicos

por qué no se puede introducir en lanbide con criterio general para cualquier tipo de fraude para cualquier tipo de ciudadano

y esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla

es porque hay falta de voluntad política o no hasta el día de hoy esa falta de voluntad política se ha constatado en las propias declaraciones

responsables públicos entre otros del propio consejero no creo que la introducción de herramientas que

los problemas en la gestión de colas en la gestión de documentación en la gestión de identidades sea ningún problema porque lo que mi grupo defiende es que se introduzcan pero se apliquen para todos igual para todo el mundo igual lo que no puede seguir

es que encontremos los días pares en los medios de comunicación noticias como la de hoy de que efectivamente hay quien sabe

que con normalidad se escandalizan porque las cantidades son importantes de cómo una misma persona puede engañar a lanbide y cobrar varias rgi sea esta persona

de nacionalidad nigeriana o de ocho apellidos vascos lo reitero por tercera vez espero que en esto no haya dudas a mí me importa un pepino el color de la piel

lo que quiero es que efectivamente lanbide sea riguroso las herramientas que introducen las nuevas tecnologías son para todos los ciudadanos

para acceder a sus puestos de trabajo me parece especialmente relevante porque lo he leído en algunas de las enmiendas que no exista estigmatización alguna como no existe estigmatización alguna en la aplicación de una fórmula como esta en

va a utilizar como método de acceso en su fórmula

espero que ninguno de ellos considere eso y que ningún ciudadano tampoco lo considere como decía los días pares noticias de identidades falsas en lanbide cobrando dos tres cuatro cinco seis siete y hasta diez veces

noticias de que efectivamente existen sistemas y procedimientos para evitar esos fraudes

a día de hoy todos los grupos de esta cámara excepto el mío están diciendo no que no es que esta cosa que dice

pues que no que esto es una cosa que no se puede aplicar porque estigmatiza

y yo creo que efectivamente debemos dar un paso adelante

el paso de reconocer que las cosas se pueden hacer mejor de

que estamos hablando de una herramienta para todo tipo de perceptor sea quien sea y lo vuelvo a subrayar para todo tipo de perceptor sea quien sea porque no se pregunta a un funcionario municipal para acceder al ayuntamiento

es para todo el mundo porque es un sistema mejor más rápido más eficiente y además de una forma también evidente se constata que con todos esos recursos que diariamente salen publicados y todos los recursos que diariamente no salen publicados y se están produciendo

a muchas más personas yo creo sinceramente que en este momento de dificultades la solidaridad de lanbide debe extenderse debe haber más casos

y los recursos son limitados aunque la rgi sea un derecho subjetivo debemos fórmulas para ello creo que no debe ser el parlamento vasco el que determine

de que la introducirá como se ha introducido en los teléfonos digitales como se ha introducido en los sistemas de identificación de la administración pública

por eso estoy convencido de que se hará solo depende de la voluntad política la voluntad política de una cámara que tiene que entender que las cosas son y también de la voluntad política de una cámara y de un gobierno que debe entender que si existen herramientas para mejorar la gestión aplíquense vamos a dejar de coger el problema y meterlo debajo de un cajón e insisto la noticia de hoy la que se ha publicado pero hubiese dicho exactamente lo mismo de cualquier otra noticia de cualquier otro beneficiario del servicio vasco de empleo sea quien sea porque esto es para todos absolutamente para todos espero

este mensaje que por cierto es un mensaje de máximo sentido común

en el mejor de los tonos porque creo que es completamente necesario abordar este debate con rigor y espero que en ese sentido esta iniciativa sea respaldada y podamos mañana explicar a los ciudadanos que sí

pero que como en otras tantas cosas esta cámara entiende que hay soluciones

sea quien sea el que lo comete sea el color de la piel el que sea y sea cual sea el apellido que tenga ese receptor de las ayudas sociales y hacer eso solo es hacer un lanbide mejor una gestión más eficaz de los recursos públicos por eso

es ese porque solo es ese esta iniciativa debería salir aprobada por unanimidad muchísimas gracias eskerrik asko maroto jauna

señor maroto se ha dejado el boli no es suyo señor maroto

metido en esta cruzada ya lo hizo cuando se registraron aquí las firmas de la iniciativa popular y está claro que usted ha venido a esta cámara

usted nos acaba de demostrar que está haciendo una campaña electoral su discurso es incendiario es irresponsable y además

el hecho de que una persona cometa un delito un fraude o una extorsión

un fraude también fiscal no hace culpable al resto señor maroto y es evidente que la policía está trabajando y está detectando todo tipo de casos porque noticias en la prensa hay todos los días ustedes los señores del partido popular y las señoras no los leen entonces

diciendo lo que tenemos que decir que el sistema de protección vasco ha permitido reducir la pobreza en euskadi en un cuarenta por ciento impidiendo que miles de personas

y esto no es baladí señor maroto estamos hablando de pobreza su eficiencia y eficacia así como la valoración del mismo

hay muchas personas que se quedan fuera del sistema que no solicitan la ayuda pese a su precaria situación porque desconocen que tienen derecho a ella usted no habla lo cierto es que la crisis económica y la aplicación de la reforma laboral han propiciado el incremento del número de personas en desempleo

y salarios bajos en definitiva se evidencia cada día más la escasez y la ausencia de ingresos por rentas de trabajo en muchos hogares vascos

resaltar que la mayor vulnerabilidad sabe usted dónde se da en los hogares con niños y esto a usted también le debiera de dar

ante la actual coyuntura económica es importante que nos preocupemos precisamente en conocer cuántas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión y cómo se están intentando resolver su situación en lanbide y en los servicios sociales de base nos debieran de llevar a la reflexión y al debate político para alcanzar un consenso en torno a los ajustes que necesita el sistema de protección social vasco y no

artificial e interesada sobre las ayudas sociales que de forma planificada de forma planificada se arbitran bajo espurios intereses electorales señor maroto que no llevan más que a enfrentar a unos ciudadanos con otros este parlamento lo que tiene que hacer

y no dejarse arrastrar por intereses electorales señor maroto eso es lo que tiene que hacer este parlamento este parlamento lo que debe de reconocer es que existe un problema acuciante

y vascas que padecen ausencia de bienestar le parece poco un veintidós coma siete por ciento de la población y ciento setenta y siete mil en riesgo de exclusión social de pobreza

y estamos hablando de personas señor maroto de personas en la exposición de motivos de su iniciativa que hoy debatimos

evidentemente y en este sentido sería interesante que usted

y quiénes forman parte de ella sería interesante así mismo asevera que las nuevas tecnologías mejoran la prestación del servicio público evidentemente y en todos los ámbitos de actuación

pero matiza que es solo para los casos en los que se considere necesario usted no habla de ocho apellidos vascos ustedes deciden dónde cuándo y en base a qué criterios es o no es necesario aplicar

y usted aquí no ha contado toda la verdad usted ha cambiado el discurso amparándose en una noticia y le ha dado la vuelta pero eso no es lo que viene usted diciendo de antes hasta ahora manifiestan también en la exposición de motivos

de la gestión económica de los recursos públicos sin embargo en la parte dispositiva solicitan al gobierno vasco la implantación de la huella digital como sistema de reconocimiento para un colectivo concreto

y estigmatiza y esa es la realidad se da cuenta señor maroto que usted lleva meses cuestionando a los pobres y estigmatizando a ciertos colectivos que ustedes plantean certificados de pobreza y huellas digitales para las personas que menos recursos tienen mientras aplican amnistías fiscales

ustedes marginan a quienes más sufren a personas que quieren trabajar y sin embargo se han visto abocados

con dignidad estamos viendo cuáles son los postulados del partido popular ustedes plantean vuelvo a decir certificados de pobreza huellas digitales para ciertos colectivos

un planteamiento contrario a la legislación vigente porque limita a la libre circulación de las personas señor maroto lo lógico es plantear la huella digital a todas las personas preceptoras de ayudas sociales

que a los beneficiarios de la sanidad pública o de la educación o de cualquiera de las prestaciones del estado o de la administración pública

hoy mismo es la fecha límite para que los clientes de las entidades financieras lleven su dni para ser digitalizado operación

y esta medida afecta a todas las personas sin excepción y la ciudadanía está cumpliendo con esa obligación legal sin cuestionar ni estigmatizar a nadie

la legalidad vigente y por establecer sistemas de control por qué no se disciplina usted mismo para controlar su trabajo como alcalde tiene usted a muchas personas esperando

con los abusos como el de los locales de san antonio

o el intento de contratar ilegalmente a una persona en la empresa etcétera etcétera

por usted mismo antes de cuestionar y estigmatizar a ciertos colectivos termino poniendo en valor el acuerdo que hemos alcanzado con el grupo nacionalistas vascos

ambos grupos y que voy a terminar leyendo en primer lugar el parlamento vasco reconoce

de las medidas adoptadas en esta larga y profunda crisis y defiende el sistema público de protección social como herramienta de solidaridad y cohesión para que nadie que lo necesite

por ello rechaza cualquier intento de instrumentalización partidaria

ahí está la clave estigmatizaciones de colectivos o cualquier otro elemento que enfrente a la ciudadanía que pasa necesidades que solo pretende debilitar recorta el sistema de protección social y rompe los equilibrios de la sociedad tolerante solidaria construida en las tres últimas décadas en segundo lugar el parlamento vasco insta al gobierno vasco a mejorar y a agilizar el funcionamiento de lanbide para una tramitación más eficaz de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda

para impedir que ninguna persona que de despojada de sus mínimos ingresos de dignidad para ello pide al gobierno vasco que dote de los recursos de control necesarios

los expedientes correspondientes y su verificación y por último el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que siga realizando cuantos trabajos estudios e informes estimen necesarios para modernizar y actualizar los sistemas de identificación

ante la administración pública para todas las personas señor maroto para todas las personas sin que su implantación estigmatice a ningún colectivo por nuestra parte

estigmatizatzeko estamos a favor del progreso de la utilización de los avances técnicos que favorezcan la relación más ágil

entre la administración y la ciudadanía pero con igual rotundidad nos manifestamos en contra de la utilización de dichos medios para estigmatizar y controlar

concretos es evidente que el partido popular con su pnl

como ha venido haciendo hasta ahora desde julio pasado a los y las perceptoras de la renta de garantía de ingresos se les pretende estigmatizar

que existe el efecto llamada y que las personas deciden venir a vivir a euskadi es por la existencia

pero no es que se pretenda es que se viene diciendo por varios representantes del partido popular señor maroto se lo hemos dicho una y mil veces

tenemos un sistema de protección social pionero que viene logrando una sociedad cohesionada o cuando menos mucho más cohesionada que si dicho sistema no existiera

todos los medios técnicos que mejoren la calidad del servicio y de relación

bienvenidos sean pero sin ninguna estigmatización insistimos

puede ser una forma de identificarnos ante la administración pero se pueden y deben dar pasos previos para asegurarnos su buen funcionamiento antes de ponerlo en marcha para identificar a las personas perceptoras de rgi que no podemos olvidar

en su totalidad que merece especial protección por parte de la administración no queremos entrar en su juego señor maroto de hacer creer a la ciudadanía

y que comete fraude no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad hemos firmado una enmienda transaccional con el partido socialista que esperamos obtenga el respaldo mayoritario de la cámara y que ha sido repartido y además

y el grupo socialista y votaré a favor de ella está comprobando señor maroto cuál es el problema está teniendo

de cuál es el problema que usted ha generado se sitúa ya en la realidad en la que vive comprueba usted cuál es el escenario que ha fabricado

sabe cuál es el problema que usted ya no tiene ningún tipo de credibilidad sobre esta cuestión el asunto es que usted ha envenenado el debate y lo ha hecho conscientemente por un puñado de votos y porque lleva en campaña electoral ocho nueve diez meses ese es el problema el problema es que ya no se puede ni siquiera debatir sobre la cuestión

determinadas iniciativas para luchar contra el fraude en las ayudas sociales aunque el fraude sea ínfimo ya ni siquiera eso se puede porque usted ha contaminado el debate

la convivencia este es el escenario que usted quería posiblemente sí y estos son los frutos que usted recoge que los partidos políticos de este parlamento ni siquiera quieren firmar con usted cosa parecida a lo que han firmado el grupo nacionalista y el grupo socialista que no quieren ni siquiera hablar con usted

porque usted no tiene ninguna credibilidad porque usted ha incendiado conscientemente el debate a propósito por un puñado de votos y este es por lo tanto el resultado esto es lo que usted ha conseguido

para recuperar la credibilidad que no sé si en algún momento de su carrera política tuvo lo digo francamente no sé si tuvo esa credibilidad no lo sé lo ignoro para recuperar esa credibilidad

pedir perdón públicamente por las barbaridades que ha venido diciendo durante todos estos meses todos estos meses ha venido incendiando

debería hacer es pedir perdón pedir disculpas y sumarse si quiere al consenso del resto de grupos para trabajar en común y de la convivencia esto es lo que usted debería hacer durante todos estos meses ha realizado declaraciones irresponsables demagógicas y populistas y sí ha promovido voluntariamente la estigmatización de determinados colectivos a los que inicialmente señaló como responsables existente ha empleado la exageración e incluso la mentira el cinismo político más rancio es lo que usted ha venido empleando durante todos estos meses

usted acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar y de vivir de las ayudas sociales lo dijo así literalmente por eso ya no le creemos lo que usted pueda decir hoy nadie le cree ya porque ya sabemos qué es lo que dijo antes lo que usted proponía y lo que pretendía usted dijo que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar usted y ustedes

hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes en estos términos se expresaron cuando ustedes me decían cuál cuál qué es lo que ha dicho todo esto es lo que ustedes

voluntariamente y en vez de promover esos prejuicios y realizar estas declaraciones yo creo que todo representante político lo que debería hacer es impulsar la integración y la cohesión social en lugar de romperla por lo tanto usted ha incendiado la convivencia a estigmatizado a determinados colectivos de inmigrantes

el racismo como instrumento político señor maroto en el siglo veintiuno en la euskadi actual del año dos mil quince ha utilizado el racismo y la xenofobia para conseguir

unos cuantos miles de votos no merece la pena ganar así unas elecciones señor maroto no merece la pena usted ha alentado el miedo al diferente ha jugado sucio políticamente y en ese sentido señor maroto el daño ya está hecho

seguramente coser las costuras de la convivencia

incorporarse al debate sosegado racional y constructivo con el resto de este parlamento esto es lo que usted debería hacer pero podemos hablar de fraude señor maroto y de corrupción política

cuantos miles de euros defraudados sabe cuánto cuesta la corrupción política en españa según un estudio reciente realizado por una universidad cuarenta mil millónes de euros es el coste

política en españa protagonizada por personas y ciudadanos españoles autóctonos y muchos de ellos miembros del partido popular no unos cuantos miles de euros no tres o cuatro millónes de euros no cuarenta mil euros es el coste de la corrupción política en españa y a usted no se le conoce declaración sobre la cuestión ni propuesta alguna para acabar con todos esos hechos yo al menos no se lo he oído plantear

hablemos señor maroto de los jetas hablemos de los defraudadores fiscales hablemos de bárcenas hablemos de los sobresueldos

hablemos de bankia hablemos de caja madrid hablemos de las tarjetas opacas hablemos de granados hablemos de rato hablemos de

hablemos de tantos otros hablemos de los que han saqueado durante los últimos años hablemos de ustedes y hablemos también de los partidos políticos que no han movido un dedo sino todo lo contrario para acabar con la corrupción política hablemos de los partidos políticos que han protegido a sus corruptos de todo esto se podría hablar y usted nunca ha hablado de esto nunca ha hablado del gran fraude masivo que ha habido en los últimos tiempos consecuencia de la corrupción política

por un puñado de votos insultando a la ciudadanía y estigmatizando a personas que conviven con nosotros y que por lo tanto son

nosotros en definitiva todo esto no se puede esconder señor maroto ni meter debajo de la alfombra pero usted ya digo no habla de ello ni habla

en españa por lo tanto en fin señor maroto yo casi si es que ni pensaba intervenir únicamente iba a decir que votaba a favor de la transaccional y punto

mantiene su discurso sigue en campaña creo que el acto que tenía hoy de precampaña electoral debía ser este pero en fin

pedir perdón reconocer los errores retirar esas declaraciones que ha venido realizando y sumarse al consenso sumarse al debate sosegado tranquilo constructivo en positivo sobre la rgi y

pero en positivo construyendo algo entre todos no haciendo demagogia barata porque los resultados luego son los que son la ruptura de la convivencia

entre conciudadanos y eso es ciertamente muy triste eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

jasan egin dugu en este mismo lugar hemos sido testigos de cómo el señor maroto no se ha ruborizado al utilizar datos

y al engañar vilmente cada vez que ha interpretado su papel de abanderado denomina lucha contra el fraude en lanbide cuando creíamos que no se le podía antojar algo más

sorpresa registra esta proposición no de ley eta zer bururatu zaio

a usted lo que de verdad le importa un pimiento es lanbide su función y lo que es peor

las personas usuarias de este servicios parece que para usted porque lo dice en su justificación

mire en euskal herria bildu tenemos claro que entre nosotros y nosotras hay personas que necesitan acudir a lanbide

y punto sin excepciones quién es esa gente que de verdad lo necesita es que hay gente que no lo necesita de verdad cuánta gente

usted vuelve a hacer una criba elige a los que le molestan

e intenta sacarlos del sistema y todo con un único fin como le han dicho los que me han precedido ganar votos y para lograr su objetivo no le importa enfrentar a la sociedad

enfrentar a los que peor lo están pasando porque aquí dice usted que trata a todo el mundo por igual pero en los medios de comunicación ha dicho lo que ha dicho

pero deje de manipular y deje de ensuciar lo que hoy por hoy tenemos nosotras y nosotros somos los primeros que queremos acabar con el fraude

que supone el ocho coma cinco por ciento del producto interior bruto queremos acabar también con el fraude político queremos ir contra todas esas personas

queremos ver como los defraudadores de traje y corbata pagan por sus delitos porque esos sí que causan un daño tremendo a esta sociedad porque todos y todas estamos siendo perjudicadas por sus actuaciones usted no

usted dice que quiere acabar con el fraude en el cobro de las prestaciones sociales que supone un cero coma tres por ciento entre los más de ciento treinta mil perceptores y perceptoras de rgi

en muchos casos hay mala gestión y con todo esto usted ha conseguido poner a todo el mundo en su contra la sociedad se ha levantado

representantes de la iglesia se le han revelado incluso se ha atrevido a recriminar a un representante de cáritas porque sus palabras en un acto público

a conectar la tableta en esta ocasión

aludida para leer el twit que más veces

el que más veces he trasladado a quien me lo preguntaba hasta el punto de que fue publicado en los medios de comunicación esto es lo que pienso lo que digo lo que creo

escribo son siete puntos uno

a nadie dos inmigrante no es igual a fraude

tres los abusos en las ayudas sociales también se cometen por personas nacionales ese fraude ha de perseguirse y evitarse de igual manera cuatro pido que se elimine el fraude y los abusos reconocidos por todos en la rgi no pido que se elimine

cinco no planteo ningún recorte de derechos exijo que el dinero de los abusos se dedique a ampliar la cobertura de quien lo necesita seis la corrupción en la política incluida la del partido popular

me repugnan igual o más que el fraude en las ayudas sociales siete negar los datos oficiales publicados de los abusos o decir

a cambiar la ley de la rgi genera frustración y tensión

no lo puedo decir más claro en relación al asunto de hoy por supuesto que estamos solicitando que si se introduce la huella digital

según se pueda ir introduciendo porque técnicamente tiene sus dificultades vamos a ver pero qué pasa con el dni pero es que el dni

con la huella con la huella dactilar en él es para todo el mundo o es que alguien ha pensado que alguien pudiese plantear un dni

para algunos para los hombres para los morenos

y alguien todos ustedes los setenta y cinco cuando han introducido en las

y han colocado su huella dactilar se han sentido estigmatizados

usted es un supuesto ladrón y vamos a tener aquí su huella por si acaso

para tener autentificado a todo el mundo estoy hablando solo de eso solo

es evidente que los sistemas de nuevas tecnologías deberán incorporarse para mejorar los sistemas de la administración pública

por qué no va a poder identificar a cualquiera sea quien sea este un perceptor

pero no estamos detectando que existen problemas de una persona varias
mesedez no estamos diciendo que da igual quien sea ese que tiene una única persona

si es de nigeria de argelia o de muskiz que me da igual que lo que pretendo es evitar lo que todos sabemos que pasa bien bueno

el mismo día que se están descubriendo nuevos casos de ciudadanos que falsifican pasaportes para cobrar

el mismo día que lo estoy planteando cuál es la solución que es

una persona una identidad ustedes me dicen que lo que yo planteo es incendiario

en contra bueno yo no lo puedo explicar más claro que cada ciudadano saque su propia conclusión muchísimas gracias eskerrik asko maroto jauna

señor maroto reconoce esta firma es la suya voy a leer la propuesta el parlamento vasco

inicien la implantación de la huella digital de lanbide como sistema de reconocimiento de los usuarios de la rgi

en los que técnica y jurídicamente se considere necesario con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido usted no pide

mire señor maroto usted es como aquel señor que circulaba por la autopista y de repente

uno pero si son miles pues a usted le pasa igual

usted está actuando como ariete del partido popular y usted está yendo en contra de los servicios sociales

no le gustan señor maroto en este parlamento que usted no estuvo pero hubiera estado bien que hubiera estado en la comisión de empleo y política sociales cuando comparecieron personas muy relevantes

que es el responsable del área de estadística del departamento de empleo y políticas sociales

director del centro de documentación y estudios siis la fundación eguía careaga

e iñigo calvo profesores de la universidad de deusto y representantes

y todos ellos pusieron en valor el sistema de protección social vasca hablaron su reversión en la economía vasca de forma muy positiva y coincidieron

desde su inicio ha estado sometido a un alto nivel de control sin embargo sí pusieron en el punto de mira el elevado fraude fiscal del que usted no habla

cuestionando una y otra vez la información aportada

paralelamente usted como alcalde oculto deliberadamente memorias del dos mil doce y dos mil trece correspondientes a las ayudas sociales señor maroto

una y otra vez al gobierno vasco y por otra parte al maroto alcalde que no aporta ni un solo dato a los grupos de la oposición en el ayuntamiento de vitoria

y en esa comisión han comparecido importantes expertos en servicios sociales del país vasco

y le puedo decir señor maroto alguna de las personas que han comparecido doctores en antropología portavoces de varias ongs caritas

sacerdotes que trabajan a pie de calle con quienes peor lo pasan el ex alcalde josé ángel cuerda quienes coordinaron el traspaso de lanbide

en contra de usted y he de decirle una cosa y con ello voy a terminar los profesionales y técnicos de los servicios sociales del ayuntamiento de vitoria gasteiz evidenciaron

un discurso lleno de errores y distorsiones y todos estos son todas las personas que van en dirección contraria a la que va usted lo lógico es que usted reflexionará y pensase que lo lógico es que este parlamento

sobre las personas que peor lo están pasando y cuáles son las necesidades que no están cubiertas y desde luego si hay que hacer ajustes en el sistema de protección social hagámoslo pero con un debate

incendiando porque eso no es creíble y usted ha evidenciado hoy que

su debate con una noticia que por cierto evidencia el trabajo policial y que los controles se están llevando a cabo y le vuelvo a repetir los delitos corresponden a las personas con nombres y apellidos no a colectivos ni a organizaciones ni siquiera a personas que sean del mismo color como ha dicho usted de las personas y por eso usted que entra en contradicciones en lo que ha dicho aquí hoy meter en un todo porque una persona cometa un fraude un delito fiscal una extorsión un asesinato porque eso se llama estigmatizar señor maroto

legebiltzarburu andrea ha modificado su tono señor maroto decía venir en actitud conciliadora pero creo que se lo ha dicho otra representante a mí me ha parecido que era un lobo con piel de cordero

y la verdad que es que no merece ninguna credibilidad su discurso pero por sus propios hechos y actitudes en el pasado llevan desde hace diez meses desde

y la verdad que la cercanía de elecciones municipales ahora pues a nosotros nos hace dudar mucho de sus intenciones creemos que lo está haciendo como le han dicho otras representantes

de votos nos resultan palabras huecas

que no creen no creen porque no es eso lo que han estado manifestando y que en este momento haya cambiado de rumbo

la verdad que este cambio de rumbo si no es porque tenemos elecciones dentro de menos de un mes que nadie lo entiende nos parece cero seriedad cero sinceridad cero credibilidad y hablando de elecciones

que gasteiz que había sido un ejemplo de solidaridad

conocida por todos y por todas por esa solidaridad y reconocida por ello

de todos por todo lo contrario por el ambiente xenófobo y racista que se ha creado impulsado

irresponsables que se han venido repitiendo y repitiendo en los últimos diez meses

a nuestro juicio usted va a dejar el ayuntamiento de gasteiz con el baldón de haber fracturado a la sociedad vitoriana con haber roto la convivencia y no solo lo décimos nosotros es que

las personas que hemos intervenido en este debate y la verdad que con ese discurso contrario a la solidaridad que insisto es la que había venido caracterizando a esta ciudad de gasteiz y que nos da

usted haya roto toda esa solidaridad y toda esa cohesión

consenso que había a favor del sistema de protección que teníamos y que seguimos teniendo en euskadi y que

en romper y estoy de acuerdo también cuando se habla de incorporarnos sosegado y tranquilo no lo décimos hoy lo hemos venido diciendo en muchos de los debates que hemos tenido relacionados con este tema pero creemos que debiera de ser fuera del periodo electoral porque no creemos que las posturas en este caso sean sinceras

todo el mundo está aquí intentando buscar un puñado de votos podemos hablar de lo que sea lo hemos dicho para mejorar para evitar los fraudes para que insistimos es ínfimo

lo dicen pero todo este debate ha de producirse fuera del periodo electoral y la verdad que es una pena

porque en nada favorecen a esta ciudad ni a las personas

no recule si usted presentó esta proposición no de ley y al de poquitos días

hablando acusando a un colectivo en concreto se evitarán casos como la trama paquistaní de qué estamos hablando pero qué

proposición no de ley es que en la justificación también dice

de la identidad de algunos perceptores de la rgi

la tesis que usted utiliza cuando habla de lanbide de derechos sociales

se le ha quedado en nada porque usted sabe mejor que nadie

eso sí que se ha guardado en un cajón un informe que encargaron en el ayuntamiento de gasteiz

y que se ha callado por mucho que se lo hayan pedido los grupos de la oposición y por qué se ha callado por qué no ha hablado de ese informe porque ese informe dice y habla de la necesidad de combatir los estereotipos falsos

trescientos páginas que recomiendan trabajar por la cohesión social por tanto aunque se lo he dicho en más de una ocasión su propuesta su debate

a vuelto a utilizar este parlamento para iniciar su campaña electoral y lo ha hecho como ya nos tiene acostumbrados enfarragando los derechos sociales decía otra portavoz que hay gente que se queda fuera del sistema claro

acercar un servicio social de base si tiene una cruz así en la frente cómo

eso es lo que usted está consiguiendo por eso hoy no vamos a votar a favor por supuesto ni de la propuesta inicial ni del acuerdo que aquí se ha llegado viniendo de quien viene la propuesta inicial estando en las fechas en las que estamos pues como comprenderá esto no nos merece ninguna credibilidad y no hemos debatido en serio sobre lanbide no hemos debatido en serio sobre el problema que existe en lanbide no hemos debatido en serio

coberturas sociales y no vamos a entrar en este juego por eso vamos a botar en contra